mahaiburu andrea el diálogo social para nosotros es un instrumento para reforzar y dotar de mayor eficacia si cabe

y está basado en la posibilidad de alcanzar un consenso que sea compartido entre los diferentes sectores sociales creemos

formalmente la mesa de diálogo social por ello pasado el siete de julio tenemos la intención de convocar esa mesa

no dudo de la sensibilidad que tiene usted y su gobierno con la mesa con el diálogo social pero nosotros podíamos haber planteado la pregunta en un tono más quirúrgico tal como si está el gobierno dispuesto a cumplir los mandatos de este parlamento pero

más suaves de momento usted me dice que no se va a poder cumplir el mandato porque el periodo de sesiones

y lo que tampoco entendemos es que lo quiera llevar más allá del siete de julio cuando esa fecha umbral se presenta precisamente como una fecha crítica para los trabajadores que quedarán sin convenio colectivo usted dice que no se dan las condiciones bueno realmente

de todo tipo claro si nosotros apelamos al pasado parece que tratamos de poner en valor lo que hicimos y que en fin respiramos por la herida y todo este tipo de cosas

con las mismas dificultades que hoy se convocó se abrió la mesa de diálogo social por supuesto también fue objeto de críticas ya conocidas que no reproduciré

que hicieron mejorar las condiciones

y no estuvo exenta de críticas esa mesa de diálogo social pero pese a las críticas pese a las estrategias de algunas organizaciones sindicales que están en su derecho

se convocó se abrió y se puso en marcha y se llegaron a acuerdos

que el gobierno gobierno que por cierto ha puesto como

compromiso con las personas en el día de ayer ya veíamos que el compromiso del gobierno

parece que el gobierno está más comprometido con algunas organizaciones sindicales y con su estrategia que con las personas porque la fecha crítica del siete de julio afectará a personas por eso en fin tenemos que decir en primer término que lamentamos mucho que el gobierno ya no vaya a cumplir con ese mandato parlamentario

un comportamiento poco apropiado como mínimo segundo dice usted que después del siete de julio tampoco entendemos que después del siete de julio se vayan a crear las condiciones

creemos que esa respuesta en todo caso es dilatoria quiere plantear el asunto más allá del periodo de sesiones para que ya quizás

este parlamentario es bastante tenaz en este asunto ya sea después de las vacaciones creemos que la urgencia del asunto es ahora y le emplazamos a que lo haga si puede ser
en el periodo de sesiones para poder cumplir con el mandato parlamentario y nada más eskerrik asko

le dije un día itxaso que conmigo iba a poder estar de acuerdo o en desacuerdo

de usted depende que se lo crea o no me sorprende señor itxaso

a usted personalmente de manera pormenorizada las conversaciones que estábamos manteniendo con todos y cada uno de los agentes sociales más de treinta reuniones para abordar una salida consensuada a la situación generada con la negociación colectiva

no ha parado no ha parado en la búsqueda de un acuerdo en defensa de la negociación colectiva de carácter provincial y en aras de prolongar la efectividad de los convenios lo hemos explicado también en esta tribuna nuestro objetivo ha sido trabajar

porque creíamos que era la mejor estrategia para conseguir un resultado favorable para la negociación colectiva y para que no se quebrara una confianza que a nuestro juicio estaba ya excesivamente debilitada lo importante

si efectivamente hay espacios de encuentro entre los agentes sociales y el gobierno más de treinta le repito yo le invito señor itxaso de verdad

y seamos capaces de profundizar en los contenidos materiales en definitiva puede haber mesa sin diálogo social

o lo que es lo mismo lo importante es el diálogo no la mesa tal es así

nos ha solicitado la convocatoria de la mesa de diálogo social a nuestro entender porque se estaba dando un marco de relación satisfactorio y adecuado en el momento en el que nos encontrábamos señor itxaso

ser capaces de lograr un acuerdo antes del siete de julio y en eso estamos involucrados y la mesa de diálogo social créame y sabe usted igual que yo que no hubiera servido para eso lo importante el grave problema que tiene este país en este momento en las relaciones laborales de este país tiene que ver con el siete de julio con la ultractividad

con la posibilidad de un acuerdo interprofesional y en eso estamos trabajando y lo importante señor itxaso es que ese acuerdo se produzca con mesa

ojalá se produzca y si se produce celebrémoslo todos sin que nadie nos atribuyamos quizá aquello que no nos corresponde pero dejemos

y posibilitemos también ese cauce para que las partes

de ese posible acuerdo lo puedan desarrollar en las mejores condiciones posibles y usted sabe que una mesa de diálogo social convocada en ese momento

se produjo la transferencia de la inspección de trabajo al gobierno vasco de conformidad con lo dispuesto en el decreto de transferencias de veintiocho de junio de dos mil once desde el momento de la transferencia al personal transferido se le ha aplicado una retribución de forma transitoria

recogiendo por un lado una retribución individual y personal en el decreto de transferencias y complementariamente aplicando el acuerdo transitorio de abono de salarios aprobado

por el que se disponía la publicación del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación entre los sindicatos y el gobierno vasco de veinte de enero de dos mil doce dichos acuerdos

hasta en tanto no se apruebe la rpt en el momento en que esta se apruebe

se dará a la rpt efectos retroactivos a uno de enero del dos mil doce regularizándose así la retribución del personal transferido en dicha fecha el trámite de la rpt de este personal

del año pasado del dos mil doce quedando finalizado todos los trámites en función pública

a falta de la contestación a los recursos interpuestos contra el perfil lingüístico de un puesto de trabajo los cuales fueron contestados estos recursos

desde esta fecha el proceso está completamente finalizado y pendiente solo para su aprobación de su remisión al consejo de gobierno por esa razón y en nombre de los socialistas vascos

cuándo tiene previsto su departamento y función pública elevar al consejo de gobierno la aprobación de la rpt

bai legebiltzar buru andrea como usted bien sabe señora sánchez esta es una tarea

pendiente por el gobierno anterior y que nosotros hemos tomado como no podía ser de otra manera para culminarla en estos momentos está en plena fase de tramitación no está parado desde febrero del dos mil trece está en plena fase de tramitación

que va a estar lista para su aprobación en el consejo de gobierno durante el próximo mes de julio eskerrik asko aburto jauna

señor consejero yo me alegro y sería deseable desde luego que la aprobación de la rpt se haga a la mayor brevedad posible y eso por una serie de razones en el momento de la transferencia se tuvo en cuenta para

se tendrían que aplicar las retribuciones correspondientes al año dos mil diez ya que el decreto de transferencias se publicó en junio del dos mil once no se podía hacer de otra forma porque había que recoger de una forma completa el último año abonado antes de la transferencia

problemas los inspectores de trabajo que se incorporaron nuevos durante el año dos mil diez durante el primer año reciben retribuciones inferiores esas retribuciones al año de prestar servicio se regularizan en el dos mil once las tenían regularizadas

volvieron otra vez a ser abonados conforme a la retribución de recién incorporados en el año dos mil diez y no se puede volver a regularizar hasta que no se aprueba la relación de puestos de trabajo por otra parte todos los inspectores

no pueden recibir su retribución completa porque existe también un problema con la aplicación del complemento de productividad al existir una diferencia entre la estructura retributiva existente en el ministerio de trabajo y la existente en el gobierno vasco y por último además

existentes en nuestra comunidad autónoma dentro de la inspección de trabajo por eso

lo que le solicitamos es que se regularice la situación del personal cuanto antes ojalá sea en el mes de julio

y regularizar la situación de este personal muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko

como usted bien sabe señora sánchez se han producido incorporaciones durante este periodo

en que vacantes que existen puedan cubrirse y por lo tanto vamos a hacer

esté aprobado esa relación de puestos de trabajo la inspección de trabajo y seguridad social fue objeto de transferencia

ochocientos noventa y cinco barra dos mil once de veinticuatro de junio y decreto del gobierno vasco ciento treinta y ocho barra dos mil once de veintiocho de junio estableciéndose que en la fecha de efectos de esa transferencia fuera la de uno uno dos mil doce tal y como usted ha señalado el anterior equipo de gobierno inició la tramitación

que conforman el servicio de inspección de trabajo con la intención manifestada de tener concluida la relación de puestos de trabajo del personal transferido

del año dos mil doce una relación de puestos de trabajo es el instrumento más importante de gestión de una plantilla

complicado por eso está llevando más tiempo del que seguramente el anterior gobierno preveía la tramitación del procedimiento de elaboración de la relación de puestos por lo tanto se está prolongando más allá del tiempo inicialmente previsto durante

no se pudo concluir esa tramitación se hicieron y se pusieron las condiciones para que

avanzara esa tramitación ha avanzado y espero que pueda concluir

una toma en consideración de cómo estaba la tramitación del procedimiento para proceder a continuación a proseguir con aquellos trámites que todavía estaban pendientes y poder concluir finalmente el proceso ello ha supuesto tal y como usted también ha señalado tener que recibir y valorar el informe de la viceconsejería de política lingüística sobre los perfiles de los puestos de trabajo

a esta administración así como a efectuar una adecuación también de los niveles profesionales del personal de estructura de la inspección de trabajo

con la estructura y competencias funcionales del personal que presta sus servicios en el gobierno vasco en función de su propia relación de puestos de trabajo

mejor dicho de función pública que han culminado recientemente se han realizado todos los trámites preceptivos que conlleva el procedimiento para la redacción

creemos que podría aprobarse por parte del consejo de gobierno antes de finalizar el mes de julio y espero que así sea eskerrik asko

con la excusa de la crisis económica los distintos últimos gobiernos han tomado en los últimos años decisiones que han llevado a importantes reducciones salariales a todos los trabajadores de la administración

están llevando a cabo otras medidas de recortes que afectan directamente a los usuarios en unos casos y a los trabajadores en otros sin embargo los directivos de osakidetza siguen cobrando un incentivo que dependiendo de su puesto

euros anuales se da el caso de que varios de estos directivos de hospitales cobran sumando el sueldo y el incentivo más que sus jefes directos en concreto

y los directores de asistencia sanitaria económico financiera y recursos humanos a nosotros esto nos parece un privilegio y queremos

número de altos cargos y dirigentes de la sanidad pública vasca cobren unos incentivos por hacer su trabajo por cumplir con la función para la que han sido elegidos

justificación ni razón objetiva alguna y estos privilegios que se aplican desde hace años se siguen manteniendo ahora en plena crisis económica cuando el gobierno está tomando decisiones que suponen sensibles recortes sociales para todos los ciudadanos

de la administración podemos citar que dentro de diez días entrará en vigor el copago farmacéutico aunque no es responsabilidad de su gobierno la bajada de sueldos que se arrastra durante los últimos años aumentos de jornada

la drástica reducción de las inversiones también o la disminución significativa en las partidas de investigación es decir se impulsan una serie de recortes pero se mantienen

que no están en absoluto justificados a pesar de esta situación económica lo cierto es que ciento quince directivos y responsables del sistema sanitario vasco mantienen unos complementos que van como digo de los nueve mil quinientos cincuenta a los

cuando se está recortando el sueldo a los funcionarios cuando se está bajando las partidas de inversión e investigación y cuando se recortan los derechos sanitarios de los ciudadanos es

es inaceptable que este gobierno mantenga unos privilegios para sus altos directivos para algunos de sus directivos una prueba más de este sin sentido es que gracias a los incentivos hay varios directores

euros cantidad que nosotros consideramos significativa

lo que alguna vez hemos oído para justificarlos que es difícil encontrar directivos competentes si no se les paga esos sobresueldos no nos parece que sea una justificación no la admitimos si eso fuera cierto habría que pagar incentivos y complementos a todos los directivos de la administración y de sus organismos en fin

hay básicamente dos tipos de incentivos unos de once mil cuatrocientos sesenta euros anuales y otros nueve mil quinientos cincuenta euros anuales cosas ciertamente curiosas al analizar esta lista como usted mismo reconocía en la comparecencia en la que presentó el proyecto de presupuestos para su departamento es curioso que los responsables de una determinada comarca como la de uribe cobren menos que los del resto de comarcas lo que da una idea de la arbitrariedad

en fin que así un largo catálogo de arbitrariedades que no

ya denunciamos durante el debate del frustrado presupuesto durante su comparecencia estos hechos usted efectivamente afirmó que iban a estudiar el asunto que iban a revisar incentivos han pasado ya unos cuantos meses queremos saber cuál es la decisión del gobierno qué es exactamente lo que va a hacer usted efectivamente hablaba de situación

habrá que corregirla y queremos saber exactamente qué es lo que ustedes proponen para corregir esa situación gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok señor maneiro como usted mismo reconoce en la formulación de la interpelación uno de los temas que el gobierno a propuesta de este departamento va a poner encima de la mesa en el planteamiento de los próximos presupuestos

que con diversas modificaciones se aplica al menos desde el año dos mil dos

al menos desde hace doce años como también expusimos en la presentación de las líneas generales del departamento de salud para esta legislatura uno de los objetivos prioritarios es el de acometer la definición de nuevas estructuras directivas

en concreto de las líneas definidas en el marco de la llamada atención integrada como principio fundamental de la organización de los cuidados sanitarios

de estas estructuras directivas ya que la integración implica la creación de estructuras comunes

y por lo tanto se plantea menor número de directivos y de organizaciones de servicios en este momento

durante la presentación del proyecto de presupuestos para dos mil trece la configuración de los salarios de los directivos de osakidetza y en concordancia con lo que he expuesto hasta ahora

nuestro propósito es suprimir los incentivos para establecer un modelo de retribución por puesto directivo que permita a los profesionales

acceder a una retribución equitativa dentro del marco

pública vasca pero permítame que le transmita también que no entendemos que tienen ningún privilegio antes de la implantación

del modelo de retribución actual de los directivos se disminuyó su banda salarial fija para poner una parte variable que en ningún caso

o sea que no han tenido un privilegio simplemente han tenido una redistribución de nómina y se lo digo desde al menos los últimos doce años gaur egun

es por coherencia señoría por lo que estamos valorando cambiar la situación actual

es un modelo de retribución heredado también recordar

al acceder al puesto directivo dejan de cobrar el complemento de carrera profesional un complemento retributivo sustancial esto quiere decir que un profesional deja su puesto de trabajo habitual para asumir una responsabilidad y gana un salario menor

al que venía percibiendo estoy seguro de que usted entiende perfectamente que en estas condiciones es difícil pedir a los profesionales que den un paso adelante se comprometan y asuman mayor responsabilidad lo cual requiere un importante esfuerzo laboral y personal

que a todos los directivos de osakidetza se les han aplicado

y congelaciones salariales que al resto de los trabajadores de la administración durante los últimos años

en cuanto a las sustituciones que me plantea también ni ahora ni en períodos y legislaturas anteriores se han sustituido a los directivos de las organizaciones sanitarias durante sus ausencias o permisos siendo asumidas sus funciones

de la misma organización volviendo a lo concreto de la aplicación o no de retribución variable la previsión que manejamos

aplicable al año dos mil trece tabla que como no puede ser de otro modo cumplirá estrictamente el imperativo legal que determina el artículo cuatro punto uno de la ley catorce barra ochenta y ocho de veintiocho de octubre de retribuciones de altos cargos

la modificación del sistema retributivo de los cargos directivos de osakidetza llevará aparejadas las modificaciones normativas correspondientes

que en el marco fijado resulten suficientemente equitativas para asumir las necesidades de dedicación y competencia inherentes a un puesto de dirección en las organizaciones de servicios

en su modificación pero tampoco vamos a engañarnos ni tratar de engañar a nadie con medias verdades propondremos sueldos justos y acordes con el esfuerzo la responsabilidad y la dedicación de los cargos a desempeñar siempre alineados con la ley

consejero nos parece muy bien que ustedes vayan a plantear

sueldos justos para una serie de personas que realizan por supuesto un trabajo muy importante

esto de que el gobierno eso de que el gobierno anunció en la comparecencia la reformulación de la retribución variable y la revisión de este sistema de incentivos

que les preguntó sobre esta cuestión en concreto qué iba a pasar con ello

yo le pregunté y usted respondió esto de que nosotros el gobierno anunciamos en la comparecencia la revisión de este sistema me parece un poco exagerado

nos parece bien la reformulación de la retribución variable se aplica desde el año dos mil dos es un modelo heredado

bien y muy correcto que ustedes vayan a disminuir el número de directivos y nos parece muy bien que se encuentre en un periodo de estudio de la configuración de los salarios en todo caso nosotros lo que proponemos es la supresión

supresión de los incentivos y presentaremos también la correspondiente moción para que pueda ser debatida en cuanto se inicie el nuevo periodo de sesiones quizás ahí

del grupo que apoya al gobierno y del propio gobierno en todo caso nosotros propondremos la supresión

y sueldos justos pero sin ningún tipo de privilegios en nuestra opinión lo que ha habido hasta ahora han sido privilegios evidentemente

entenderse o no cada uno tendrá su opinión en nuestra opinión estos son

es una situación anómala como usted mismo reconoció y por lo tanto independientemente de que esto sea una herencia de gobiernos anteriores esto hay que cambiarlo y nosotros propondremos cambiarlo a través de la correspondiente moción que presentaremos no lo sé si este gobierno pensaba

esta propuesta pero lo que sí está claro es que el partido nacionalista vasco criticó durante largo tiempo el mantenimiento de estos incentivos y por lo tanto por coherencia lo que nosotros esperábamos es que este gobierno pues

en cuanto llegó al gobierno pues una de las primeras medidas que tomara fuera precisamente esta no lo ha hecho

cuanto antes nosotros estaremos vigilantes y estaremos atentos gracias eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko darpón jaunak dauka hitza

bueno puede usted aceptar mi palabra o no pero créame que

que fue la contestación mía a una formulación de su pregunta como

como estábamos con la firme idea de modificar

que fue francamente criticado por nuestro grupo parlamentario en la legislatura anterior la palabra privilegios es una palabra que quedará bien para la galería

del hospital de cruces su sueldo sea el número doscientos cincuenta entre el total de médicos del hospital de cruces pues yo perdóneme no lo veo así el del hospital de araba sea doscientos cuarenta y siete y el del hospital de basurto se lo digo de memoria y no me estoy equivocando en doscientos setenta y seis

no parece un privilegio las retribuciones que cobran los directivos de osakidetza

son en su mayoría sueldos acordes a la responsabilidad y dedicación en los puestos que requieren

es el hecho en sí mismo de que una parte de los salarios sea a través de incentivos lo que debe y va a ser corregido con moción

que no compartimos la filosofía de los incentivos pero también transmitir que es cierto

de las empresas de nuestro país y de nuestro entorno es variable y sujeta al cumplimiento de objetivos barbaridad entendemos que tampoco ha sido para finalizar quiero recordarle

ha cobrado ni un solo céntimo por este concepto zentimo bakarra

buenos días a todos a nadie en esta cámara le sorprenderá que hoy preguntemos de nuevo al gobierno

los socialistas los venimos haciendo a ritmo casi mensual

a través de la prensa desde el minuto uno de la legislatura nos hemos interesado por algo

y lo hemos hecho como décimos con preguntas escritas orales proposiciones no de ley etcétera y ese interés es verdad que en algunos momentos

expresión que no hemos entendido nunca aplicada al ejercicio de la labor del control

sí pero para los bolsillos de los ciudadanos pero este fin de semana oyendo la radio pública vasca hemos oído que ya estaba todo hecho que en julio empiezan a aplicar el copago

para poder aplicar dicho copago que se han producido aplicaciones que impiden que se pueda cargar a un paciente

y para evitar devoluciones posteriores todo eso lo supimos por el saludable hábito de poner la radio el lunes también a través de otros métodos como por ejemplo

el consejo de gobierno daría cuenta de esta decisión y así fue según la documentación remitida igualmente a la prensa que no a esta cámara hay una gran noticia y leo textualmente la nota de prensa

el denominado copago farmacéutico en todo caso aplicará la medida de la forma menos perjudicial posible para la ciudadanía vasca

tengo que decir que me parece muy complicado presentar como algo positivo algo que de entrada es lesivo para los derechos de los ciudadanos aunque haya que aplicarlo por imperativo legal

la oposición del gabinete urkullu a esta medida impuesta por el gobierno de mariano rajoy

ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en euskadi que será de hecho la última comunidad autónoma de todo el estado en implantarla

cuánta beligerancia ha presentado este gobierno a las medidas impuestas por el gobierno de rajoy dónde hay un recurso de inconstitucionalidad por ejemplo contra la ley de tasas

este gobierno ha hecho cero oposición a las medidas de rajoy cero oposición discursos sí pero medidas ninguna

para decir que no les gusta lo que tienen que hacer pero que lo hacen

hacer uso del autogobierno para defender los intereses de los ciudadanos vascos y el estado de bienestar

y al decreto de copago le constó ni más ni menos que perder los apoyos parlamentarios para seguir gobernando y es en ese escenario en el que no encontraron

esta es la oposición que ha realizado el pnv no al gobierno de españa sino a los intereses de los vascos y nos encontramos con la paradoja de que ahora incluso se presentan como los campeones del rechazo a los recortes por resumir

que hizo todo lo que estaba en su mano para impedir el repago el gobierno de urkullu en cambio ha aplicado

nada innovador es verdad que han establecido el límite automático del copago para evitar que los pacientes tengan que reclamar

pero tampoco es ser innovadores ya lo hacen otras comunidades autónomas y aplaudimos también sin rubor

para que los ciudadanos conozcan exactamente cómo les va a afectar esta medida en su vida en unos meses pero también le reprochamos con contundencia

eludido deliberadamente dar explicaciones a esta cámara que le ha venido reclamando estos datos de forma reiterada

intente presentar como logros de este gobierno las exenciones y límites del copago que en realidad son la mera aplicación directa del decreto porque eso es falsear la realidad y en consecuencia incumplir una vez más

pero lo que le reprochamos por encima de todo lo demás es que hayan renunciado

en el cargo a acompañar la debida y obligada implantación del repago con medidas de compensación a los colectivos vulnerables estamos una vez más hablando que desde el día uno de julio

van a tener que pagar por medicinas que hasta el día de hoy no pagaban y de ellos el setenta por ciento

van a cobrar y cobran menos de dieciocho mil euros al año

lo que significa hombres y mujeres mayores de sesenta y cinco años

con una o varias enfermedades y si encima en el grupo familiar hay más de un enfermo hablamos del doble de gasto

por tanto si hay un segundo miembro de la familia que en ese colectivo es bastante fácil pues

el paciente toma algún medicamento hoy desfinanciado esto ya no es responsabilidad del gobierno vasco pero quiero hacerle ver la vulnerabilidad de este colectivo

el recargo que tiene este colectivo si además debe tomar algún medicamento desfinanciado

y encima estamos hablando de personas que la pérdida real del poder adquisitivo por la no actualización de esas pensiones

consecuencias del paro de sus hijos por lo tanto y a este colectivo como décimos

les añadimos este repago y por todo ello esas cantidades que se ahorran y que apenas alivian en las cargas públicas son para

pueden ser el ver restringido el derecho a la salud

le hemos instado a buscar medidas de compensación hemos planteado la posibilidad que lo que se ahorra el departamento pueda ser también destinado a esa propia compensación entra por un lado y sale por otro

va a otro lado le hemos sugerido también sino que se acompañen de otras instituciones o que analicen vías fiscales de compensación para eso tenemos el autogobierno

y además los socialistas le hemos ofrecido el apoyo para encontrar soluciones pero la respuesta constante de su departamento ha sido por el momento

nos lo han dicho en plenos ordinarios y en los de control el pasado mes de marzo

vamos a conseguir que nadie se quede sin un medicamento porque no disponga de medios para ellos cómo lo van a conseguir quiere usted explicárnoslo a esta cámara porque

la intención de esta interpelación conocer si ustedes han encontrado una fórmula para compensar

la colaboración por pago o el repago farmacéutico que usted se concentre en los más vulnerables usted el gobierno

pero quisiera comenzar mi intervención señalando una vez más que no estamos de acuerdo con la implantación del copago en euskadi por mucho que usted se empeñe en negarlo es una medida que no apoya ni el departamento de salud ni el gobierno vasco en su conjunto para nosotros es una medida innecesaria lo hemos dicho en innumerables ocasiones y se lo voy a reiterar ez gaude kopagoaren alde ez da

con un tercio del presupuesto del gobierno vasco para preservar el sistema sanitario como público y de calidad es decir con tres mil doscientos sesenta y tres millónes de euros de presupuesto no creemos

vaya a mejorar sustancialmente el servicio que prestamos en la pasada legislatura señora roncal apoyamos el recurso que ustedes presentaron ante la implantación del copago

hoy seguimos pensando que el copago es una medida innecesaria pero no podemos ser insumisos ni hacer demagogia nosotros también tendremos que aplicar la ley solo que euskadi lo hará un año más tarde que el resto de las comunidades autónomas y lo vamos a hacer a partir del uno de julio

nuestra principal preocupación a diferencia de lo que sucede en otras comunidades las personas pensionistas que alcancen el tope de aportación por mes no tendrán que adelantar más dinero y esperar a que les sea reembolsado con posterioridad

dejarán de pagar cuando lleguen a esa cifra máxima así mismo el copago se implantará a la vez en los tres territorios y en todas las farmacias

vamos a limitar a la mínima expresión la necesidad de utilizar reintegros de gastos en primer lugar porque no queremos marear al ciudadano y hacerle la vida más complicada

a los empleados públicos un trabajo sin valor añadido para el ciudadano y así señorías no aportamos nada ni avanzamos hobeto

para implantar el sistema informático y así ha sido

para agradecer públicamente a los colegios de farmacéuticos y a las farmacias vascas su colaboración y disposición para que esta implantación de la nueva aportación farmacéutica sea lo más fácil

eskerrik asko zuen laguntzagatik por lo tanto dijimos que el copago lo implantaríamos en seis meses aproximadamente antes del verano y así se ha hecho

queríamos un sistema que fuera lo menos lesivo para el ciudadano y así se ha diseñado y se va a desplegar no hemos sido esquivos hemos sido responsables

que sería el gobierno quien informaría a la ciudadanía de la fecha exacta de la implantación

cuando dije en el fórum europa que sería el gobierno vasco en el momento preciso quien lo haría

nos hubiera aportado algo anunciar hace un par de meses que íbamos a implantar el copago el uno de julio sinceramente

por otra parte la implantación tal y como la tenemos prevista tiene una gran complejidad técnica

ha llevado su tiempo y su incertidumbre respecto a la fecha de inicio también para nosotros

para empezar con la implantación a comienzos de mes sin esperar a agosto porque no nos hemos escondido dijimos que no seríamos insumisos que aplicaríamos la ley y que asumiríamos nuestra responsabilidad y hemos hecho lo que dijimos

diciendo qué es lo que harían o dejarían de hacer es muy fácil hacer declaraciones cuando no se tiene responsabilidades de gobierno porque lo que no entendemos

ningún fondo económico para llevar a cabo las compensaciones de las que se está hablando ahora también nos sorprende que un partido de ámbito estatal no tenga el mismo criterio para el conjunto del estado es decir que lo que se defiende en euskadi

euskadi no tiene precisamente las pensiones más bajas del estado y sin embargo hemos hecho lo posible para que nuestros pensionistas no tengan que adelantar

dinero a veces por periodos de medio año sino que sus gobernantes ni se planteen un fondo de compensación para ellos no lo entiendo sinceramente

creo que también hemos hecho un ejercicio de responsabilidad a la hora de anunciar la recaudación

que entre dieciséis y veinte millónes de euros pero habrá que esperar hasta avanzar en la aplicación para estar seguros se trata de una medida nueva a la hora de hacer estas estimaciones hemos tenido en cuenta la desfinanciación de determinados medicamentos en el último trimestre

no son fácilmente comparables además es muy probable

entre en vigor una orden nueva de precios de referencia

por lo tanto la cifra que hicimos pública en el consejo de gobierno es una simulación respecto al gasto real de los primeros meses de este año en euskadi

las recetas tendrán un código tsi de aportación

y las personas usuarias deberán abonar el porcentaje asociado

que depende de su situación sociolaboral y del nivel de renta

y sus beneficiarios pagaban el cuarenta por ciento del precio de los medicamentos adquiridos con receta oficial ahora quienes tengan rentas por

seguirán costeándose cuarenta por ciento si superan esa cifra pagarán el cincuenta por ciento

pagarán el sesenta por ciento en el caso de las personas pensionistas el régimen será diferente con carácter general pagarán el diez por ciento del precio del medicamento con un tope mensual por persona establecido en función de su renta

pagarán un máximo de ocho euros catorce céntimos por persona y mes

pagarán dieciocho euros con treinta y dos céntimos por persona y mes

ese tope asciende a sesenta y uno euros con ocho céntimos por persona y mes

una vez alcanzados esos topes no deberán pagar ni un céntimo más para estar seguros de la aportación que le corresponde a cada uno y si se ha superado el tope mensual

los farmacéuticos tendrán constancia fidedigna de esta información en todos los casos

los siguientes colectivos personas con discapacidad contemplado en la normativa específica perceptores de renta de garantía de ingresos

personas paradas de larga duración cuando se les haya agotado el subsidio

y enfermedad profesional y personas afectadas por el síndrome tóxico y para recordarle a la memoria le voy a leer

de un diario de implantación en nuestra comunidad donde la anterior directora de farmacia nos decía el doce de agosto

y que ya habíamos tenido ocasión de leer dice usted que sabia hace dos meses en qué fecha iba a poner en práctica

vale de todas maneras y luego reprocha al anterior gobierno que no hubiera dejado un fondo económico mire usted el anterior gobierno

de inconstitucionalidad presentado y ganado que le ha dado a usted tiempo organizar las cosas y hacerlas y poner en práctica el copago cuando le ha convenido por tanto el gobierno anterior le dejó unos deberes bastante bien hechos y por otro lado yo no sé aquí qué pretende usted explicar

basta que lo que usted deja de pagar a las farmacias lo revierta a los colectivos vulnerables

no va a ingresar ningún dinero por el copago se va a ahorrar un gasto pues ese dinero que queda en sanidad que lo revierta a los colectivos vulnerables no hace falta ampliar el presupuesto

oiga la misma pero señor consejero usted no me va a enredar en este debate no me va a tomar el pelo usted falta

usted gobierna y la oposición le pregunta por lo que hace y por lo que no hace y usted debe responder ante esta cámara es una cosa inventada hace mucho tiempo se llama democracia y se llama control del legislativo al ejecutivo pero vuelvo a decir no me voy a enredar en esta disputa con usted de lo que se trata ahora es de qué nos diga qué va a hacer para garantizar que la aplicación del copago no impida a un solo ciudadano a acceder a su derecho a la salud porque

oiga obras son amores qué obras va a hacer usted qué va a hacer usted para impedir que el colectivo más vulnerable pensionistas ese colectivo que no llega a los dieciocho mil euros al mes que no sobrepasa los dieciocho mil euros al mes y que tiene como usted sabe

incorporadas pueda mantener su acceso a la salud mediante los tratamientos farmacológicos que precise y que le prescriben sus médicos porque mire no queremos que se repita lo que hace dos semanas en esta misma cámara hizo su compañero

hizo un discurso teórico de oposición a la ley de tasas pero luego no la ha recurrido así que mientras hacía cuentas sobre los ingresos que esta medida

de quedar bien con la ciudadanía no queremos que aquí ocurra lo mismo porque además podemos hacer otra cosa se lo he señalado antes aquí se pueden arbitrar medidas de compensación por decreto

la misma que usted ha empleado para imponer a los trabajadores de osakidetza los nuevos horarios

para evitar que los vascos por lo menos los colectivos vulnerables de los que estamos hablando aquí todo el rato económica y socialmente así como los crónicos

salgan dañados con el copago inclúyalo como gasto farmacéutico en la misma partida ya se lo digo lo que se deja de gastar por un lado lo gasta en otro

que sean descontadas de las aportaciones con lo cual tampoco salen perdiendo las diputaciones busque una vía haga uso al menos de una parte de la imaginación y el tiempo

para este colectivo y si necesita un amparo legal si la situación de prórroga presupuestaria o la falta de una partida adecuada para arbitrar una solución

búsquenos a nosotros en este parlamento le comprometo aquí a mi grupo parlamentario para apoyar una ley de acompañamiento o de medidas urgentes presupuestarias para arbitrar esa vía legal le comprometo a mi grupo parlamentario para si quiere

para resolver este asunto de esta manera si usted necesitara hacer una modificación presupuestaria y le puedo comprometer a mi grupo parlamentario porque mi grupo

más aún mermados sus derechos es verdad que así lo ha decidido el gobierno de rajoy pero que lo asume sin más el gobierno de urkullu ustedes han cogido como lema

que el colectivo más vulnerable en el conjunto del estado tiene dificultades para acceder a la salud por dificultades para acceder a la prestación farmacéutica

señorías creo que toda la información de debíamos dar la hemos hecho pública con claridad

y ciudadanas cuando décimos que nuestro compromiso es con las personas lo décimos porque lo creemos vuelvo a reiterar que hemos sido responsables

estamos de acuerdo con el decreto que interpusieron el recurso que interpusieron a la ley dieciséis barra dos mil doce y así la apoyamos pero el tribunal constitucional

jokatu dugu beti bezala hemos reforzado todos nuestros canales de comunicación con la sociedad

a través de los centros de salud de las oficinas de farmacia de los hospitales de las páginas web del departamento de salud y de osakidetza de irekia

zuzenean etcétera nos hemos tomado el tiempo que dijimos para instalar un sistema informático adecuado y que en euskadi no hubiera que adelantar el dinero tal y como está sucediendo

hemos cumplido los plazos hemos hecho las cosas aceptablemente bien y con responsabilidad sin demagogias y décimos lo que pensamos primero vamos a ver cómo afecta de verdad esta medida a las personas con menos recursos al grupo de pensionistas con rentas anuales

un colectivo que no es completamente homogéneo nuestra verdadera preocupación y después y en consecuencia valoraremos las medidas que consideremos oportunos y si están

con independencia de visiones apocalípticas por los datos que se desprenden de la dirección de farmacia son pocas las personas en activo

y la mayoría de las prescripciones corresponden a analgésicos antinflamatorios y antibióticos de precios no muy elevados tampoco parece que el copago vaya a desequilibrar las cuentas de aquellos activos o pensionistas con rentas superiores a los cien mil euros que haberlos los hay

que por supuesto nos preocupan y no dudo que les preocupan a ustedes cuentan también con un gran número de fármacos con la consideración de medicamentos de aportación reducida

lo que significa que esos medicamentos que tienen que tomar tengan el precio que tengan solo tienen que pagar en su farmacia el diez por ciento con la cuantía máxima de cuatro

por lo tanto nuestra mayor preocupación y donde vamos a centrar el foco una vez puesto en marcha

pero esperaremos unos meses para valorar cuál es el impacto real

y en función de eso si es preciso tomaremos medidas aldez aurretik ez ditugu erabakiak hartuko ez dut uste bide egokia denik hori nuestra preocupación es la misma simplemente nosotros tenemos la decisión de ver primero cómo les afecta

valernos de la experiencia de otras comunidades autónomas porque ninguna y repito ninguna tiene en marcha medidas compensatorias para estos pensionistas

y que en algunas comunidades ustedes gobiernan por lo tanto vuelvo a repetir

y fuera otra no lo entiendo ez dut ulertzen ezin da ulertu finalizo

primera vamos a aplicar el copago el uno de julio asumiendo la responsabilidad que nos toca y sin hacer demagogia

segunda lo vamos a implantar mediante el sistema que hemos considerado menos lesivo para los ciudadanos y ciudadanas en euskadi

ez tercero valoraremos posteriormente cómo influye el copago al conjunto de los ciudadanos más afectados y en consecuencia obraremos cójame la palabra en consecuencia obraremos con responsabilidad y con la verdad por delante la cantidad máxima que van a tener que pagar los pensionistas que cobren menos de dieciocho mil euros es

el equivalente a seis barras de pan pero estén seguros que esto no nos quita porque si tenemos que poner el foco en aquellas situaciones más difíciles
lo haremos porque sinceramente este gobierno no necesita lecciones de políticas socialeseste gobierno no eskerrik asko

barkatu es normal a estas horas son muchas preguntas supongo que estarán ustedes también cansados como yo

comparecieron ante la comisión de salud para presentar el borrador del plan funcional

en el transcurso de esta comparecencia el señor viñagra dijo que uno de los objetivos de este proyecto

a las necesidades de atención especializada de los y las alavesas tratando no solo al paciente agudo sino también a aquellas personas consideradas como crónicos también señaló que a lo largo de esta legislatura o en una o en ambas sedes

para tratar a personas con este tipo de necesidades en el proyecto actual del hua se abordan diversas estrategias de tratamiento de pacientes crónicos

entre ellas están la potenciación de la estrategia

la utilización de la telemedicina y los programas de autocuidado una concertación de camas

sesenta y tres camas y las unidades específicas que se generarán dentro del mismo hua que serán una unidad de pacientes frágiles

del papel de la atención primaria en este campo su potenciación

que permite reducir ingresos hospitalarios y atender en muchas casos a las personas en su domicilio

en la evolución de esta enfermedad de todas formas señora garrido como conoce

señalaron que en este plan no se solucionaría la problemática global de crónicos y que en consecuencia habría que hacer un plan definitivo

en primer lugar se reconoce que existe un problema sin solucionar con este tipo de enfermos y que no se resuelve con la presentación del citado plan funcional el propio consejero usted mismo en la presentación de las líneas generales de su departamento reconocía es cierto que álava necesita

algo tendrán que decir al respecto aquellos es decir el partido nacionalista vasco en este caso que han tenido responsabilidades de gobierno durante treinta años añadían

pero si no tenemos disponibilidad para construir pues inicialmente

ser vía concertación esto también lo decía usted en esa comparecencia

para pacientes mayores de vitoria gasteiz no es la más adecuada siempre ha sido el partido popular el que ha defendido la necesidad de una infraestructura específica para los crónicos

ahora parece que lo reconoce aunque con una absoluta confusión y desorientación a la hora de ofrecer soluciones en la presentación del citado plan funcional se nos decía por un lado que el hua es un hospital enfocado a agudos

en las dos sedes luego se nos dijo que este plan no resuelve la problemática global de los crónicos y que habría que hacer un plan definitivo de crónicos

que es el objeto de esta iniciativa por lo tanto señor consejero reconocen que la solución puesta encima de la mesa no es definitiva en consecuencia es un mero parcheo el plan anunciado para esta legislatura

ahora entienden que es la solución definitiva qué solución se plantea entonces para cuándo por qué no nos la plantean ahora y por qué esperar

en relación a dar una solución definitiva a la problemática de crónicos primero usted mismo hablaba de concertación solo de concertación luego de camas

y ahora nos hablan de un plan definitivo para dar respuesta a las necesidades de estos enfermos a lo largo de esta legislatura quieren vendernos dar a entender que aportan soluciones

de verdad para resolver las necesidades de hospitalización de los enfermos crónicos las necesidades de hospitalización que tenemos pendientes para estos enfermos

hablamos de una infraestructura específica no solo con camas sino con servicios específicos como hospitalización consultas externas especializadas rehabilitación hospital de día no nos presente como novedosa unas soluciones que no son novedosas no nos diga que va a habilitar camas en santiago y en txagorritxu cuando ya hay camas que se utilizan para este tipo de enfermos

la discriminación respecto a nuestros vecinos vizcaínos

y bilbaínos se produce una discriminación cuando los ciudadanos de vitoria los pacientes de vitoria se tienen que trasladar a leza con el perjuicio

sino a sus familias y usted además lo ha reconocido en reiteradas soluciones

para la problemática de los enfermos crónicos en vitoria eskerrik asko garrido andrea eta erantzuteko darpón jaunak dauka hitza

hay que escuchar mire usted la geografía de euskadi

gipuzkoa y en bizkaia hay muchas poblaciones a más de una horade distancia de los hospitales de crónicos allí ubicados

le dijimos que nos gustaría tener disposición de camas de crónicos en vitoria gasteiz

y también le voy a decir si sabe usted de algún enfermo crónico de álava que esté mal atendido deme el nombre y apellidos porque estoy dispuesto a estudiar el caso de forma individual así mismo de forma individual en álava tenemos camas en leza

y las hemos tenido los últimos treinta años y tienen la dificultad de la distancia

no es una tragedia en un momento económico difícil además tenemos una concertación en san onofré en el centro de la ciudad y además vamos a prever de camas antes del final de la legislatura

donde los tenemos en txagorritxu o santiago

por otro lado no se sorprenderá usted porque como estaba previsto en la anterior legislatura

y luego no le quepa a usted ninguna duda que nuestra prioridad en inversión sanitaria en álava para esta legislatura

zurea da hitza sí gracias señor
las asociaciones de diabéticos han denunciado recientemente que el departamento de salud dispensa un número insuficiente de agujas para inyectarse las dosis necesarias de insulina para hacer frente a su enfermedad en concreto afirman que reciben cincuenta y cuatro

sesenta y seis de un solo uso por lo que se ven obligados a reutilizarlas o a comprarlas ellos mismos la federación de diabéticos considera que esto es una mala práctica que está prohibida por el ministerio de sanidad la unión europea y la organización mundial de la salud y por eso exige a su departamento

para no verse obligados a reutilizarlas en euskadi según los datos de la propia federación

deben inyectarse insulina diariamente y lo hacen dos coma dos veces al día de media

dispensa mensualmente unos kits que incluyen cincuenta y cuatro agujas desechables cuando necesitan sesenta y seis la federación denuncia que las agujas reutilizadas pierden su esterilidad y sus puntas se van deteriorando

pueden romperse al volverse más frágiles y pierden precisión al administrar las dosis exactas requeridas en cada ocasión lo que puede provocar

pérdidas de visión daños renales úlceras en la piel

por eso le preguntamos señor consejero si va a modificar esta política y suministrará las agujas suficientes para que los enfermos no tengan que reutilizarlas adaptándose a lo que dicen los organismos nacionales e internacionales la federación de diabéticos españoles

ante los tribunales si no erradica una práctica prohibida por el ministerio la unión europea y la organización mundial de la salud los representantes de este colectivo dicen ellos han intentado en vano reunirse con usted

incluso en la guía práctica clínica utilizada por los sanitarios recomienda esta práctica ilegal de reutilización de las agujas siempre que la destreza de los pacientes lo permita aseguraba el presidente de la asociación de diabéticos de euskadi señor

confiesan que confían en recibir una respuesta positiva

después del verano para evitar una denuncia ante los tribunales

desde la asociación de euskadi han denunciado además

al no atender algunas de las demandas de los niños afectados por diabetes como las agujas especiales para niños o los bolígrafos de medias dosis

si usas en los pequeños agujas normales los atraviesas los padres se encuentran con muchas complicaciones para tratar a los pequeños y casi siempre tienen que comprar el material porque el que proporciona osakidetza es inadecuado esto denunciaba el señor obviamente señor consejero no soy entendido en la materia

estas personas ciertamente están preocupadas por la situación y al parecer y por lo que han dicho quieren reunirse con usted y al parecer usted no les ha respondido estas personas quieren por lo tanto soluciones y ya digo puesto que al parecer usted no quiere reunirse con estas personas lo que yo hago es

para que usted pueda dar las explicaciones que considere en fin espero que pueda tranquilizarles a través de la respuesta que dará